en el primer punto le instamos al gobierno vasco a negociar y acordar

la suficiencia de recursos humanos en el servicio vasco de salud para garantizar la asistencia sanitaria universal equitativa y de calidad adoptando para ello cuantas decisiones sean necesarias la convocatoria de una ope que fije como meta recuperar los puestos de trabajo destruidos los últimos años y que garantice la estabilidad de la plantilla

para un incremento de las tasas de reposición que garantice la cobertura de las bajas por jubilación incapacidades permanentes o fallecimientos al cien por ciento tercer punto que elabore un plan de empleo para osakidetza a medio y largo plazo

a las demandas de servicios actuales y garantizando el relevo generacional y evitando el envejecimiento de la plantilla cuarto punto recuperar el espíritu de consenso y acuerdo del año dos mil que permitió

entre el gobierno y la totalidad de los sindicatos quinto punto poner en marcha medidas de fomento del empleo cumpliendo todas las sustituciones desde el primer día y en todas las sustituciones y sexto punto analizar las situaciones de empleo eventual al objeto de transformar en estructurales todas aquellas que lleven tal situación tres años o más eskatuko genukeena da

gracias presidenta buenos días a todas y a todos podemos compartir que es fundamental para garantizar una atención sanitaria

de unos recursos humanos adecuados en el sistema público de salud

motivación y adecuadas condiciones de trabajo facilitando para ello al personal sanitario los medios para que puedan prestar la mejor atención posible

fundamentales prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos y mantener unos puestos de trabajo públicos dignos con condiciones laborales y medios suficientes que les permitan a estos trabajadores realizar correctamente su trabajo sin embargo existen distintos problemas

perjudican y lastran a consecución de estos dos objetivos y el gobierno vasco debería tratar de resolver

para lograr la consecución de estos dos objetivos que nosotros consideramos fundamentales y desde luego para seguir contando con un sistema sanitario universal

seguir contando con un sistema de este tipo sino para fortalecer y mejorar el que ya tenemos y a partir de ahí eh bildu nos presenta una serie

al menos en su filosofía compartir en todo caso nosotros presentamos en su momento una enmienda de totalidad proponíamos instar al departamento de salud a presentar en el plazo de tres meses en la comisión de salud un estudio detallado de la evolución de la plantilla

y las bases sobre las que se debería configurar una próxima ope que cubra el actual déficit de plantilla así como las fechas aproximadas de celebración de esa oferta de empleo público y proponíamos también instar a osakidetza a seguir avanzando

y adoptar medidas para facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas el grupo socialista también presentó una enmienda que nosotros consideramos muy interesante y cuya filosofía podemos compartir también especialmente en lo que se refiere al punto número dos de esta iniciativa

con el gobierno central un incremento de las tasas de reposición en el sistema vasco de salud que se resuelvan a través de una ope este mismo año con el objetivo de reducir la interinidad hasta cubrir al menos las bajas por jubilación incapacidades permanentes o fallecimientos este punto de la enmienda planteada por el grupo socialista ya digo que nos parecía muy interesante aunque finalmente no se ha reflejado así en la enmienda de transacción que han firmado ambos grupos

básico fundamental indispensable necesario que el gobierno vasco negocie con el gobierno de españa sin embargo ustedes han retirado esta idea originalmente planteada con acierto por parte del grupo socialista o al menos no se detalla en estos mismos términos aunque luego obviamente

en relación a esta cuestión podemos estar de acuerdo con la filosofía por lo tanto que inspira esta iniciativa porque upyd defiende una sanidad pública y de calidad y la consecución de los dos objetivos que señalaba antes prestar óptimos servicios públicos a los ciudadanos y mantener unos puestos de trabajo dignos

decentes y medios suficientes que les permitan a estos trabajadores realizar correctamente su trabajo y lo cierto es que en los últimos años se han producido

que este gobierno como todos los gobiernos niega o renombra denominándolos ajustes indispensables para mantener los servicios públicos esenciales

que están lastrando los servicios públicos en el ámbito sanitario se ha ampliado la jornada laboral no se cubren muchas bajas y permisos

y se suspendió la carrera profesional para ahorrar entre otras medidas que según los profesionales afectan a su carga de trabajo al estrés a la hora de desarrollar su labor y sobre todo a la calidad del servicio que actualmente se presta a los pacientes

ha gozado de un amplio reconocimiento por parte de los ciudadanos vascos que han visto cómo el servicio que se prestaba en euskadi había ido mejorando paulatina y progresivamente

en los últimos ejercicios y la causa directa y real son los recortes que han impuesto no solamente el gobierno vasco sino también el gobierno de españa y a partir de ahí los propios sindicatos los propios trabajadores han venido promoviendo movilizaciones y paros cuando se impulsan recortes la calidad se resiente y es lo que está ocurriendo en estos momentos y aumenta el estrés y la presión sobre los profesionales

y aumenta la inseguridad cuando se obliga a los profesionales a rotar por distintos servicios porque no los conocen lo suficiente lo que afecta a la calidad del servicio y aumenta

que ya estaba aprobada lo que también repercute en la calidad del servicio es un cúmulo de factores que tiene una consecuencia directa la calidad

es peor que la que se ofrecía hace algunos años por tanto como primera medida deberían detenerse los recortes en el ámbito para garantizar los mejores servicios sanitarios posibles y recuperar los niveles de ejercicios anteriores también hemos defendido que periódicamente se convoquen

las bajas por jubilación fallecimiento creaciones de nuevos puestos en nuevos centros de salud hospitales etcétera

de las necesidades reales muy por detrás de lo que debería hacerse es decir podemos compartir

esta iniciativa y la transaccional que finalmente han firmado ambos grupos nosotros consideramos que los sindicatos tienen su papel y nosotros el nuestro y lo que nosotros debemos hacer es exigir y plantear

al propio departamento de salud del gobierno vasco que es el responsable último de las decisiones que se toman por eso nuestra enmienda original iba dirigida

gobierno vasco en todo caso y vistas también las enmiendas del resto de grupos ya digo que compartimos lo fundamental de lo que finalmente y especialmente compartíamos lo que proponía el grupo socialista en su segundo punto la necesidad de instar al gobierno vasco a que negocie a la mayor brevedad con el gobierno de españa un incremento de las tasas de reposición en el sistema vasco de salud que se resuelvan a través de una ope este año esto por lo tanto podemos compartirlo compartimos la necesidad de negociar por tanto con el gobierno de españa un incremento de las tasas de reposición en el sistema vasco de salud

ope es claramente insuficiente para lo que necesita nuestro sistema

y viendo la enmienda de transacción que han firmado el grupo socialista y eh bildu compartiendo en general la filosofía que impregna la misma

de instar al gobierno vasco a negociar con el gobierno de españa porque es lo que debe hacer y no le queda otra finalmente ya digo que visto lo visto y a la espera de los argumentos de los demás grupos nosotros en principio nos abstendríamos ante esta transaccional que ambos grupos han firmado

señora presidenta señoras y señores parlamentarios consejeros buenos días a todos bien mi grupo

importancia y relevancia en lo que debemos de definir como política de empleo público relacionada con la calidad de los servicios en este caso sanitarios

esta cuestión tiene que ser abordada definitivamente por el gobierno y por los agentes sociales y entendemos que el papel del parlamento debe de ser el de a que eso se produzca y conocer eso sí el proceso negociador y las consecuencias del mismo ese debe ser desde nuestro punto de vista nuestro papel gobierno y agentes sociales representantes sindicales deben de abordar este proceso con urgencia y también

superando graves desconfianzas y recelos algunos de ellos prácticamente estructurales eso sí que es una asignatura pendiente pero nosotros debemos de instar a que todo eso se supere mi grupo ha presentado una enmienda de totalidad ya que consideramos que la proposición no de ley

así dificulta el propio proceso negociador que tratamos de impulsar lo que la señora ubera nos presenta planteamientos previos de una mesa

en lo relativo a la parte sindical además que si tiene que ser un mandato parlamentario encorseta y dificulta desde nuestro punto de vista el proceso negociador

la transacción que bildu y el partido socialista han firmado que lo único que hace es apuntalar esos planteamientos encorsetadores y nosotros no consideramos que el parlamento vasco debe de convertirse en plataforma sindical y sobre todo generando

que se han planteado en algunos de sus puntos no se puede partir con un planteamiento

de cuestiones que se vean en su caso en la mesa sectorial y que sería negociadas y acomodadas a tiempos a situaciones diferentes la organización cambia y evoluciona y esa definición de cambio la tiene que analizar por supuesto el gobierno detectando necesidades y posibilidades de actuación

trasladando propuestas y reivindicaciones responsables y realistas que busquen de verdad garantizar la calidad del servicio

y la motivación y el compromiso de los trabajadores nuestra enmienda de totalidad aborda la cuestión en tres puntos cuestiones que

en este parlamento sin reglamentismos ni condiciones previas que dificulten negociaciones eso lo tenemos muy claro y nosotros por eso en nuestra enmienda en este caso será la que votemos la que defendamos instábamos al gobierno vasco a garantizar reforzar el sistema vasco de salud que deberá seguir siendo público universal y de calidad para dar respuesta a las necesidades sanitarias de toda la población de la comunidad autónoma

que tiene que garantizar todo lo demás en este caso las negociaciones laborales o de ofertas públicas de empleo también

la mesa sectorial en cuanto órgano competente para negociar las condiciones laborales

interlocución y colaboración con los trabajadores y sus representantes sindicales para en su caso esa mesa de negociación sindical ejecutiva

como cuestión importante a que se siga dotando a osakidetza de los recursos humanos y los medios económicos necesarios para garantizar precisamente todo eso de lo que hablamos todos

y a la atención sanitaria de calidad ofreciendo una cobertura pública universal tanto en el acceso como en sus prestaciones mediante

sostenibilidad del sistema vasco de salud bien cuestiones importantes básicas que desde luego no alteran y no condicionan una negociación que es lo que donde se tiene que sacar los frutos en relación con el tema y que es la asignatura pendiente

no de ley de bildu forma parte de una batería de iniciativas que tienen que ver con el empleo público la transparencia y la convocatoria de ofertas públicas de empleo que también

de este tema y en definitiva y para finalizar nosotros entendemos que nuestro planteamiento sí es

profundizar desde luego en procesos transparentes abiertos de ofertas públicas de empleo de empleo público

pero todo ello sin encorsetar ni reducir el ámbito de la negociación y siempre cumpliendo la normativa vigente nosotros somos el parlamento vasco

señora presidenta señorías buenos días a todos

no puedo empezar otra cosa sino señalarle que debería haber resumido toda esa calidad que usted desea todas esas opes y todos esos recursos de personal que dotar

con los recortes de rajoy que yo creo que eso es el resumen final en fin

en este tema ya lo dijimos en el último pleno el grupo parlamentario socialista estamos en desacuerdo con la gestión de estos dos años

y que en sanidad dirige el señor darpón por qué qué ha pasado en estos dos años

pérdida de la calidad de las condiciones laborales más horas de trabajo al año menos sueldo y en algunos casos solo congelación

negativa a abonar una carrera profesional ya negociada y aprobada comprometida no se sustituyen las bajas los fallecimientos y las incapacidades

por medidas de gestión medidas de gestión sobre la espalda de los trabajadores y no otras medidas que se pueden haber incorporado y aplicado

a perjudicar a los trabajadores de hecho todos los sindicatos se han puesto de acuerdo contra las decisiones de osakidetza y del gobierno y la gota que ha colmado el vaso evidentemente ha sido

el gobierno dice que defiende un sistema de calidad eso sí lo dicen pero

un sistema vasco sanitario de calidad se mantiene mediante inversiones en infraestructuras y equipamientos y con personal estable

motivado y preparado estable y con una carga de trabajo adecuada en este momento el porcentaje de inestabilidad es importante en osakidetza y además la carga de trabajo

no solo por el mayor número de horas anuales que tienen que trabajar sino porque cuando no se sustituye deben de asumir el trabajo del compañero

por tanto esta iniciativa tiene interés por la paralización del gobierno a parte de los discursos paralización en las acciones por eso nuestro primer punto de acuerdo con el grupo eh bildu viene a decir negociar y acordar en la mesa sectorial no décimos nosotros cuántas plazas se deben de ofertar en la ope no décimos

en la mesa sectorial con los sindicatos y acordar y negociar con ellos el número de

que resuelva varias cosas a la vez pero claro no ofertar aquello que pasivamente nos dice el gobierno de rajoy tasa de reposición del diez por ciento oiga no

de negociación para conseguir un aumento un incremento de la tasa de reposición no hemos visto eso por ningún lado y por eso le décimos paralización por eso décimos que ustedes deben hacer más cosas mucho más esfuerzo en sanidad para mantener ese sistema sanitario vasco de calidad

y que tanto apoyo ha tenido a lo largo de los años por parte de la población

es que ustedes dejen un sistema sanitario peor una herencia al siguiente gobierno peor de lo que ustedes han recibido que han recibido un sistema que a lo largo de los años se ha ido mejorando

consiguiendo una calidad más que apreciada por los ciudadanos no lo estropeen no perjudiquen el sistema sanitario de salud desde luego nuestro grupo parlamentario quiere cuidar el sistema sanitario público para que siga cumpliendo

que ha realizado hasta la fecha logrando este gran apoyo que décimos de la ciudadanía y desde luego vigilaremos y haremos todo lo posible para que usted no deje señor

por eso esta enmienda recoge en primer lugar los acuerdos sindicales en segundo lugar que haga usted un esfuerzo para conseguir

de reposición de jubilaciones bajas e invalideces que sea cercana o

usted sabe mejor que nadie y lo sabe el grupo que sostiene el gobierno que la tasa media de edad de los trabajadores de osakidetza es bastante elevada por tanto hay que pensar

rejuvenecimiento de las plantillas haga también ahí las tareas de planificar ese relevo generacional

le instamos en nuestro punto cuatro a recuperar ese espíritu de consenso del año dos mil en el que se acordaron las treinta y cinco horas y otras medidas sobre el empleo porque ustedes reconocerán como nosotros que el mayor problema que tiene en este momento el país vasco es el desempleo

y no queremos compararnos con quienes están peor lo mismo que nos comparamos en esperanza de vida o en algunas otras tasas de riqueza con

que están en mejor posición también en las condiciones laborales del sistema público queremos compararnos con los mejores no con los peores por eso no aceptamos los discursos del señor consejero cuando dice aquello de trabajan menos que otros cobran más que otros sí pero también trabajan más que otros y cobran menos que otros compárese y no nos haga trampas con los que se suele comparar siempre

ya pero calidad del trabajo como canarias en fin

en que queremos que se cuide el sistema sanitario público con inversiones y con el personal con una mejora del número de las personas pero también

porque el sistema sanitario público no solo cumple una función sanitaria de proveer un cuidado a la población de salud usted sabe que también tiene una función social y si cuidamos el empleo tendrá también un efecto anticrisis

hainbat neurri ezarri dira permítele que le recuerde señora roncal que su gobierno tanto en españa como en euskadi

rebaja salarial al personal del sector público

impusieron vía normativa básica la congelación salarial que aún sigue vigente

para la defensa de la salud pública deituriko elkarteak egindako txostenak horietan guztietan herritarrek

para responder a las necesidades de plantilla consideradas más prioritarias por la propia organización pero además

a seguir atendiendo sus necesidades de personal mediante la incorporación de profesionales en régimen de interinidad reduciendo asimismo

cubriendo así las vacantes que se van produciendo y que no pueden atenderse mediante procesos de consolidación de empleo fijo

el compromiso a aprobar una oferta de empleo público para los años dos mil catorce y dos mil quince

además de mantener los cerca de veintiséis mil puestos de trabajo en la plantilla de osakidetza

a poner en marcha una nueva oferta pública de empleo con

gracias señora presidenta señora ubera yo estoy de acuerdo con usted en que

de acuerdo y sí que es cierto que ahí algo más debe de hacer el departamento de

en la cerrazón y en la oposición sistemática y permanente

y estos debates los impulsan ustedes con una total falta de responsabilidad y de realismo

de posicionamiento sindical con nombres y apellidos no parlamentario señora ubera y además yo le tengo que decir

lo que están haciendo es regenerar la economía y crear empleo eso es lo que están haciendo llámelo usted

señora roncal usted se olvida pero se olvida

hace muy poco tiempo en el gobierno vasco hace muy poco tiempo

forma parte de sus desaciertos también forma parte de sus desaciertos es decir usted se suma a la mayoría sindical que le propone bildu y eso no está bien eso no es responsable señora roncal yo creo que no

con responsabilidad conociendo y sabiendo que se cometen errores en el gobierno que hay que hacer las cosas mejor que se puede facilitar el ámbito de la negociación pero desde luego ustedes es decir si lo que estamos ahora

además aquí en esta transacción no hay ningún punto que se inste también a los sindicatos

a realizar un ejercicio de responsabilidad también y de realismo no en su transacción

importante quizá en esta cuestión pero también hay que analizar un poco esa cuestión desde ese punto de vista no hay ningún punto que inste a los sindicatos a superar

en la transacción ni media alusión a los agentes sociales en relación con este tema a que abandonen determinadas inflexibilidades determinadas cerrazones que todos conocimos que ustedes también conocieron cuando estaban en el gobierno

no he visto nada de eso ni en esta enmienda de transacción

ninguna o sea que no es señora roncal no es señora ubera equilibrada esta transacción por eso desde luego no la vamos a apoyar y como decía antes el señor maneiro en su enmienda de totalidad ustedes hablaban de negociar

lo relativo a la tasa de reposición y ahora en la transacción todo eso ha desaparecido ya no

incumpliendo la ley también la ley básica desde luego eso de la negociación ha desaparecido y por eso si a los argumentos que le he dado antes

a mí no me importa dirigirme a los sindicatos no tengo ningún problema sabe usted que los sindicatos han pasado por la comisión de salud muchas veces y han hecho unas determinadas manifestaciones de esfuerzos naturalmente pero también han señalado

y usted cree que la función del parlamento es relacionarse con los sindicatos o hacer seguimiento de las decisiones del gobierno hacer impulso al gobierno y hacer control del gobierno a quién cree usted que tenemos que dirigirnos pues a mí me parece que fundamentalmente al gobierno

en materia de decisiones de personal no la tienen no la tienen porque han hecho todo lo contrario que han predicado no han hecho más que recortar derechos de los ciudadanos

en su papel de trabajadores recortes constantemente recortes y el de la tasa de reposición es uno de ellos y no ha desaparecido de nuestra transacción si usted lee el punto número dos dice que se abran las vías para un incremento de las tasas de reposición que garantice

abrir las vías para conseguir una tasa de reposición que garantice la cobertura de las bajas

que abra las vías consigo mismo consigo mismo no

así que no me diga usted que ha desaparecido no ha desaparecido y

tengo que decirle que nos ha hecho usted aquí un pequeño lío que yo creo que son trampas sobre qué son las interinidades qué es la plantilla estructural qué son los

los interinos y los fijos son plantilla estructural

plazas de interinos que hubieran disminuido la plantilla estructural faltaría más naturalmente que no

en los eventuales y en las sustituciones esos dos tipos de personal que colabora con los objetivos de osakidetza y contribuye a ofertar

eventuales y sustitutos ambos se han disminuido muchísimo

y desde luego los de las sustituciones porque no se sustituyen porque las tasas de reposición tampoco supongo no lo sé exactamente permitirán interinidades desde luego

entiende usted ha disminuido el colectivo de eventuales que consideraba en algunos casos que llevaba muchos años

en contratos eventuales esos son los que se han ido al paro no los fijos no la plantilla estructural

a un interino no se le puede mandar a la calle solo se va a la calle cuando viene un fijo a ocupar ese puesto así que no nos haga trampas eventuales y sustituciones han disminuido un montón

en fin volvemos a decir que hay un problema que es el de la tasa de reposición

de todos aquellos que prestan sus servicios en el sistema sanitario sean fijos sean interinos sean eventuales o sean sustitutos y también

sino realmente política y que corresponde también al parlamento es analizar qué porcentaje de eventuales llevan un montón de años trabajando como eventuales

esas plazas en estructurales contará usted con nuestro apoyo

temporal pero en ningún caso las cifras de las que hablaba usted un montón

no un montón eta

que conste en acta no no como no había finalizado el momento de votación solicito que se repita

espera a ver una tarjeta ay

muchas gracias presidenta buenos días señorías la iniciativa que traemos hoy los socialistas

o en su defecto a nosotros tampoco nos gusta mucho traerlas me refiero a la proposición no de ley que habla

declarado ese despido como improcedente se reintegren a su puesto de trabajo mientras tanto duren otras instancias

como explicábamos en la justificación este asunto trae causa de un caso de una situación que

a un trabajador de euskotren pero a pesar de que se trata de un caso concreto entendemos que tiene verdaderamente interés general creemos que este es el tipo de asuntos que encajan de lleno

por qué en primer lugar porque este es un caso y no el único de persecución y hostigamiento por razones políticas en el sector público vasco

en segundo lugar porque constituye un despilfarro arbitrario de recursos públicos y en tercer lugar

en el ámbito del sector público vasco yo no voy a relatar el proceso que se ha seguido aquí la génesis proceso en el sentido más kafkiano de la palabra y que para estas alturas ha supuesto ya más de ciento cincuenta mil euros tirados y lo que

no conformes con la primera y segunda instancia además se ve que con la pólvora del rey se puede llegar muy lejos se lleva hasta la casación es decir la persecución no tiene fin

y por qué proponemos esto y décimos que no habría por qué traer un asunto de este tipo pues porque efectivamente el estatuto básico del empleado público en en el artículo noventa y seis referido a sanciones

dice textualmente procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario

con esta previsión normativa no habría que hacer muchas conjeturas es decir aplíquese cúmplase la ley escrupulosamente aunque si eso fuera así a lo mejor este caso no habría tenido lugar por eso décimos que no había

pero claro se está utilizando la ley no para ser

ecuánime justo y para hacer un ejercicio social del derecho se está utilizando de otra manera porque se acoge la dirección de la empresa

para no obstante la declaración de improcedencia en primera y segunda instancia a mantener en casa a este trabajador mantenerlo

abonándole sí sus retribuciones que constituyen como digo a la hora de hoy un capítulo importante de recursos pero no se trata de una canonjía de una sinecura tú descansa que ya te pagamos no se trata de una figura

y además esto ha puesto en evidencia las contradicciones del propio gobierno porque en el

le preguntaba a la consejera por este asunto cómo se podía tener a un trabajador en estas circunstancias y la consejera nos decía que bueno es porque cuando se dictó sentencia el trabajador estaba de baja bueno pues esto es una contradicción muy gorda porque cuando un trabajador está de baja ni siquiera cobra el cien por ciento de su salario

íntegramente sus percepciones por lo tanto había una contradicción que pone en evidencia al propio gobierno y es por esta razón

porque demasiados asuntos sórdidos destila hoy la política como para traer este tipo de asuntos así pero tampoco lo podíamos dejar pasar porque como digo estas cuestiones tienen una lectura de indudable interés general

aseguraba prácticamente nuestra iniciativa en los términos en los que estaba ante la dificultad objetiva para oponerse a una iniciativa de sentido común

su enmienda de adición aunque se lo pague con la ingratitud porque nosotros hemos preferido transaccionar con el partido nacionalista vasco suavizando parte

de nuestras reflexiones al objeto de comprometerle en este asunto también agradezco a

su disposición a la transacción y también sus aportaciones como digo hemos querido comprometer al partido nacionalista vasco

sino que esperamos que la bancada nacionalista prestigie este parlamento

que aplique este acuerdo con la inmediatez que recoge porque a día de hoy ya no es un caso conozco por lo menos otro en la misma empresa de la misma naturaleza con otro trabajador significado en nuestro ideario político por lo tanto estaremos atentos al cumplimiento de este acuerdo

sí gracias presidenta leída

socialista leída a fondo la justificación de la iniciativa consideramos en un primer momento que efectivamente era correcto lo que se proponía pero quisimos presentar nuestra propia enmienda para

cosa que finalmente ha ocurrido con la firma de esta transaccional que ha recogido lo que pretendía ser creo yo la principal aportación de upyd

en el último punto de nuestra enmienda de totalidad cuando décimos que en el supuesto de darse circunstancias extraordinarias que aconsejasen una actuación que se apartase

la misma será resuelta mediante decisión al efecto de forma razonada y debidamente motivada informando de la misma a la representación de los trabajadores y en su caso al parlamento vasco evidentemente esto de informar al parlamento vasco puede ser considerado seguramente con acierto un exceso y por esto finalmente

esto de informar también al parlamento vasco no se ha incluido

creo que es un asunto que merece ser explicado correctamente vamos a ver

a readmitir al trabajador aunque haya recurrido la sentencia del juzgado la respuesta es que no está obligado

según lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y siete de la ley treinta y seis barra dos mil once de diez de octubre reguladora de la jurisdicción social y que dice lo siguiente

de despido o de decisión extintiva de la relación de trabajo la sentencia declare su improcedencia y el empresario que hubiera optado por la readmisión interpusiera

este vendrá obligado mientras dure la tramitación del recurso a satisfacer al recurrido la misma retribución que venía percibiendo con anterioridad a producirse aquellos hechos

a menos que el empresario prefiera hacer el abono aludido sin compensación alguna en el caso que nos ocupa el hecho de que la cualidad empresarial recaiga en una sociedad de naturaleza pública no altera lo preceptuado porque

de selección y contratación de personal laboral en todo ente público está regida por el derecho

a partir de la firma del contrato de trabajo es otro tipo de derecho el laboral el que delimita derechos y obligaciones de las partes intervinientes en el mismo por lo tanto nadie duda de que euskotren ha actuado conforme a la legislación vigente en este caso ya que la misma le da opción para actuar de la manera en que lo ha hecho

de otra manera efectivamente la opción de pagar al trabajador sin trabajar aun siendo excepcional es una opción legal tan legal como tenerle trabajando

los matices importantes en nuestra opinión son dos por una parte que se trata de una empresa pública donde el capital es público y el que actúa como empresario no está arriesgando su propiedad sino una propiedad de todos y por otra parte que en la medida en que se trata de una empresa pública es lícito

poder público se den instrucciones a los gestores de las empresas públicas al fin y al cabo los órganos directivos de las empresas públicas no son sino servidores finales del poder político atendiendo a estas dos ideas nos parece como digo legítimo pretender que el parlamento inste al gobierno vasco

en casos como el planteado de acuerdo con la reflexión anterior proponemos que la administración pública actúe de una manera determinada aquella que nos parece más razonable cuál es que los trabajadores que han ganado una sentencia y cobren su sueldo también trabajen de acuerdo con el puesto de trabajo

no décimos que eso se haga siempre de hecho en nuestra enmienda proponíamos que en los casos en los que excepcionalmente eso no sea aconsejable hacerlo se tome la decisión contraria eso sí de forma motivada y razonada era lo que nosotros planteábamos con nuestra enmienda y lo que finalmente se ha incluido en la

no instamos a que con el admitido provisionalmente se haga algo prohibido por la ley sino a que de las opciones previstas en la ley se tome salvo excepciones motivadas

opción al fin y al cabo el parlamento tiene el control político de las empresas públicas y el parlamento evidentemente no debe abdicar de ejercer su potestad sobre la cosa pública hay que tener en cuenta en el caso planteado que la sentencia es recurrible pero partiendo de la determinación de la improcedencia

por lo que no se trata de un despido provisional sino de un despido que no procedía la decisión de euskotren por lo tanto no deja de ser legal por supuesto en el caso de que no fuera legal en el caso de que fuera ilegal

ya no sería política sino que sería directamente judicial la que deberíamos emprender

lo que pretende por lo tanto es incidir en las facultades empresariales ordenando a los responsables finales de la empresa una actuación determinada en el caso de tener varias opciones

el hecho de que el parlamento pretenda impulsar medidas de actuación empresarial en las empresas públicas orientándolas de una manera determinada como lo que aquí se va a votar

e incluso como es el caso absolutamente deseable se trata de que en los casos en los que las empresas públicas haya despidos declarados improcedentes en primera instancia

que así los ha determinado se proceda a la readmisión del trabajador con prestación de servicios en lugar de optar por readmisión del trabajador sin prestación de servicios la posibilidad de abono del sueldo y cotizaciones sociales sin prestación efectiva de servicios es una novedad de la normativa laboral española

que es del empresario y que está pensada para casos extremos en los que el empresario considere que es mayor el daño

en la incorporación que el económico que se genera abonando un sueldo sin contrapartida son dos los supuestos en los que es comprensible tal decisión

en los que se impute al trabajador algún ilícito penal que no ha sido suficientemente demostrado

o en el caso de suprema arbitrariedad del empresario la experiencia nos dice que en el ámbito de la administración pública y sus empresas son más los casos segundos que los primeros

no está de más teniendo en cuenta que puede haber algún caso en el que esté justificada la decisión de abono sin prestación ya digo lo que pretendíamos incluir

brevemente el caso más claro es el despido por pillar robando a un empleado al que le han visto por las cámaras de seguridad de la empresa pero como eso no vale como prueba sino que están para otras cosas esas cámaras

y no puede usarse pero el empresario sabe a ciencia cierta que el sujeto le está robando y no quiere que vuelva a trabajar este sería uno de los casos que nosotros consideramos

en la enmienda transaccional por eso decíamos que en casos excepcionales se informe de la situación de forma motivada y razonada

detrás de la transaccional firmada por eso la hemos firmado y por eso vamos a votarla nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

eta ekimen hau aurrera ateratzea pero bueno dejando a un lado el caso concreto al que usted se refería con esta enmienda transaccional

planteada por el señor itxaso en relación con los criterios aplicar en el ámbito de la administración ppública en euskadi respeto a esa sentencia dictadas en procedimientos por despido que califiquen el despido como nulo en este caso como improcedente

la administración debe responder de manera adecuada entonces por eso compartimos el espíritu de su iniciativa y en materia de extinción de la relación laboral en el empleo público y específicamente en lo que se refiere al despido improcedente las administraciones públicas deberán aplicar la legislación laboral respeto a la extinción del contrato desarrollan los artículos cuarenta y nueve y siguientes del estatuto de los trabajadores estos es así también como dice la jurisprudencia

como consecuencia del principio de legalidad por lo tanto teniendo en cuenta lo recogido en el artículo cincuenta y seis del estatuto en el supuesto de que el despido sea declarado improcedente

entre la readmisión del trabajador o el abono de la indemnización correspondiente eso también se ha comentado anteriormente la opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo es decir según la legalidad vigente

ante la consideración del despido como improcedente la dirección de la empresa en su caso puede optar

o la readmisión en las mismas condiciones que el trabajador tenía antes de de que se produjera el despido pero además ese mismo

señala que en el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización

es decir que podemos concluir que la ley la propia ley también prioriza

por lo tanto en esta enmienda transaccional hemos querido trasladar también que nuestra opinión en aquellos casos

que resuelve la demanda laboral declare el despido como improcedente el criterio general a adoptar por la administración

de readmitir al trabajador estamos convencidos por lo tanto de que este es el criterio general que debe aplicar

y también la administración institucional se debe optar por la readmisión de la persona trabajadora independientemente

es decir hasta que la sentencia no sea firme no obstante

hemos considerado acertado incorporar el texto de la enmienda transaccional

el grupo mixto tal y como ha dicho el representante de upyd el señor maneiro puede haber algunos casos en los que haya circunstancias extraordinarias que aconsejen no aplicar el criterio general

es decir aunque se aplique el criterio de adoptar la decisión de readmitir al trabajador para determinados supuestos donde las circunstancias así lo requieran puede ser más indicado eximirle de la obligación de prestar sus servicios hasta que la sentencia adquiera firmeza

esta es una opción recogida por la legislación en el ámbito social

de la ley de la jurisdicción social contempla esa posibilidad por lo tanto como hemos dicho anteriormente nosotros abogamos porque esta opción perfectamente legal

pero entendemos que es lógico contemplarla para determinados supuestos precisamente porque puede haber cosas en los que concurran circunstancias concretas que lo justifiquen por lo tanto no hemos tenido mayor inconveniente

el señor maneiro en incorporarlo a la transacción

finalmente el último punto también como es lógico una vez que se

este criterio como general no tenemos inconveniente en que se aplique inmediatamente

muchas gracias señora presidenta señor itxaso esto

y lo que se está pidiendo aquí que se vote no es eso no es eso

a que llegan a una transacción el partido socialista y el partido nacionalista vasco en esta materia y a que soy capaz de acertar qué sale de la transacción de lo que proponen ambos partidos

al cien por ciento porque esto que ustedes nos presentan aquí no tiene nada que ver con un pobre trabajador

pero si se cumplieran la ley escrupulosamente como usted decía a la hora de contratar

procedentes o improcedentes pero como todos sabemos aquí cómo se funciona cómo se lleva contratando por el gobierno y sus diferentes organismos hace mucho tiempo por qué seguimos por ejemplo sin hay rpt de lanbide que tendrían que ser funcionarios

y claro y cuando uno ve lo que ve no solo en euskotren sino en otras sociedades públicas del gobierno vasco y al final el acuerdo al que se llega es a que sale la excepción que proponía el partido nacionalista vasco que decía que los altos cargos los contratos de alta dirección estos vamos a sacarlos no no

esos se quedan vamos a convertir en fijos a altos cargos porque sí porque se quedan queda muy bien en el segundo párrafo queda muy clarito que a reintegrar a sus puestos de trabajo inmediatamente a cualquier trabajador que este momento se halle en esa dirección

creo que hay varios creo que hay varios que pasaron de ser alto cargo del gobierno a contrato de alta dirección para luego

en este país o en funcionarios o en personal laboral fijo entrando eso sí con este con el dedo

entonces ustedes nos vienen aquí a decir que lo que hay que hacer es

descubrimos una palabra que era la funcionalización

llega a ser funcionario haya entrado como haya entrado

no aparece euskotren para nada ningún trabajador de los pequeñitos de euskotren no aparece para nada aquí aparece el gobierno vasco la administración general

todo lo que es la administración pública vasca tiene que cumplir esto que ustedes plantean aquí

yo no sé si esto responde al anexo tres famoso del pacto de los presupuestos

en el gobierno vasco pero desde luego si algo me queda claro de esta transacción es que salen dos cosas que no están incluidas

y dos que aquí hay que incorporar también a los contratos de alta dirección

y los que vamos a votar que no a algo tan loable como que los pobres trabajadores

a los puestos de trabajo porque aquí no se está discutiendo eso aquí se están discutiendo otra cosa y lo sabemos todos

nosotros no estamos por la labor de hacerles el juego eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz itxaso jauna zurea da hitza

que el asunto se originaba por un caso pero que le dábamos un carácter

porque estas prácticas entendemos que aunque surjan a partir de un supuesto concreto hay que examinarlas con ese carácter general efectivamente

lo planteaban en su momento de forma bastante gráfica persecución por motivos políticos y lo planteaba en esos términos pero no me quiero detener en el caso caso que por lo que veo además suscita más de algún apriorismo el trabajador en cuestión lleva treinta y cuatro años de servicio

típicamente de las personas que son hostigadas en su trabajo ya dejo esto a un lado para explicarle a la señora arrondo que efectivamente el último párrafo tiene lugar

porque como he dicho nosotros hemos atemperado efectivamente nuestro planteamiento inicial precisamente para poder cumplir las predicciones del señor damborenea para que se pudieran cumplir y de tal manera que lo que queremos es precisamente que este acuerdo contra la posición del partido nacionalista vasco sino que entendiera la naturaleza y el espíritu que lo anima

también he planteado el estatuto básico del empleado al que se puede acoger que le da también ese carácter

como la ley de jurisdicción social está hecha para todo el ámbito del mundo del trabajo es verdad que un empresario puede plantear eso

en este caso concreto lo que entendíamos con carácter general es que la administración

esa excepcionalidad de que en algunos supuestos pueda caber ha supuesto un caso concreto que ha descrito el señor maneiro podrían darse circunstancias en las que pero con carácter general esto no puede ser no puede ser que un trabajador esté en su casa durante tiempo porque ya

en el supremo a pesar de que precisamente desde estos ámbitos gubernamentales se entiende que el marco jurisdiccional debiera empezar y acabar aquí bueno pues ha llegado hasta el supremo esto dilata en el tiempo estas cosas

va a suponer un gasto importante y ya veremos con qué resultado y además como digo no me quiero detener en el caso pero yo lo he estudiado y lo he vivido

y eso es lo que no puede ser en el sector público vasco no se trata de un caso concreto se trata de alguno más y por lo tanto veníamos a exhortar que estas prácticas

y porque no se puede dar tampoco pie a que ciertas vendetas sindicalistas puedan cobrar carta de naturaleza esto es lo que no puede ser

y menos en estos tiempos en los que realmente es tan poco edificante la acción y la actividad política

pero tampoco podemos dejar pasar por alto estas situaciones y no porque sea un trabajador cuya significación política

porque cualquier otra persona que por sus ideas o por su trayectoria pueda ser objeto de ese tipo de acciones eso siempre es reprochable en cualquier circunstancia obviamente nosotros como no puede ser de otra manera tendremos que defender

una vez contrastadas hombre algo tendremos que hacer si eso es reprochable desde luego a mí no me importa yo creo que cualquiera lo haría porque es un caso claro

de un ejercicio completamente antisocial porque los informes de la propia inspección dicen lo que dicen eso no es una invención de nadie yo celebro señor damborenea

pero probablemente tienen que ver también con que aquí este parlamentario es predecible no es venal y por lo tanto

a poder establecer esos pronósticos nada más y muchas gracias eskerrik asko

señor itxaso por mucho que insista usted en decirnos o en intentar vendernos que esta iniciativa

no se lo cree nadie fíjese si no se lo cree nadie que la enmienda de estos señores

pero decía con una excepción los casos de contratos de alta dirección

que se quiten los contratos de alta dirección

punto porque ese es el fin de esta propuesta no es el pobre trabajador de euskotren no

y que ahora les queremos aplicar aquí medidas para los pobres trabajadores y para los pobres y esto lo sabemos todos los que estamos aquí claro y yo supongo y lo he dicho antes

por supuestísimo que es parte del anexo tres ese que no salía nunca

del pacto presupuestario del partido socialista y del partido nacionalista vasco para el año que viene porque claro

para los siguientes se podrán hacer excepciones pero los que están no esos

hay que aplicar esto ya a todos los que están las excepciones para luego a criterio del gobierno pero hoy todos los que están

incluidos los contratos de alta dirección incluidos los altos cargos reconvertidos en contratos de alta dirección

le repito que desde luego nosotros no nos vamos a prestar a esto porque si hay algo injusto sobre todo con lo que está ocurriendo y con el paro que hay es que

entrar a dedo en la administración y pretender además que eso se consolide sin dar oportunidad

porque no se convocan y no se contrata como se debe con concurso concurrencia capacidad fijándose en esas cosas y por lo tanto nosotros el partido popular del país vasco no vamos a ser cómplices

en los contratos de alta dirección eskerrik asko damborenea jauna

muy buenos días gracias señora presidenta quería empezar con una reflexión en relación a cómo somos los vascos y

solidarios somos solidarios porque es una seña de identidad de nuestra sociedad los vascos somos solidarios

de dificultad económica los vascos somos solidarios y defendemos un sistema de ayuda a las personas que peor lo están pasando precisamente utilizando recursos públicos para hacer exactamente eso apoyar a esas personas que lo pasan mal en situaciones de dificultad nuestro grupo el partido popular y yo también naturalmente como miembro de él

el actual sistema defendemos el sistema de prestaciones sociales en todas las administraciones y por tanto también el sistema de la renta de garantía de ingreso lo hacemos porque es una seña de identidad de los vascos y de las administración vasca

defender esto es también querer y saber que hay que hacer un sistema de ayudas sociales mejor o dicho de otra manera la peor manera de defender el actual sistema es

y tener una venda puesta en los ojos en este momento cambiante en muchos ámbitos donde la sociedad

habla y a veces a gritos de que hay que cambiar las cosas para hacerlas mejor

a ese debate de la misma manera que se dice que el fraude fiscal

porque asquea de la misma manera que se dice que la corrupción política repugna porque repugna también hay muchos ciudadanos que consideramos un buen sistema de ayudas sociales debe ser un sistema de ayudas sociales sin fraude y sin abusos de eso trata nuestra propuesta

trata este debate la mejor manera de poder hacerles entender después de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha escrito es tratar con la máxima humildad de reproducir aquí en esta tribuna y

algunos ejemplos de lo que opinan muchos ciudadanos del conjunto de las prestaciones sociales

de la rgi sino también de otras administraciones incluidas las municipales

que hacen y pone de manifiesto la necesidad de mejorar el sistema voy a poner diez ejemplos son diez y podían ser muchos más pero pretenden ilustrar una

de casuísticas a las que debemos los partidos políticos en todas las administraciones dar respuesta qué le podemos decir a un comerciante a un autónomo que para tratar de salvar su negocio pide un crédito a una entidad financiera y a pesar de obtener ese crédito

y quiebra su tienda quiebra su negocio y se acerca a las oficinas de lanbide para pedir una ayuda social y le dicen para ti no hay porque ese prestamo se computa como un ingreso atípico y por tanto estás fuera

una norma que en la teoría es igual para todos pero que en la práctica después no lo es qué le décimos a todos los ciudadanos que día sí y día también

por ejemplo en mi ciudad en vitoria que hay personas que por la mañana están en la oficina de lanbide pidiendo ochocientos sesenta y seis euros a los que les corresponde

con hechos evidentes contrastados confesados y en ocasiones condenados como hemos conocido en el barrio de judimendi en nuestra capital

leyendo que después de varios meses todo sigue igual y que la actual normativa permite

que escandaliza a muchos vecinos yo entre ellos sigue cobrando esa remuneración a través de las ayudas sociales qué le podemos decir a todos los

en muchas ocasiones de forma discreta supongo que el gobierno vasco también a través de informes argumentan como en demasiadas ocasiones una noche sí

y la manera de identificarse es con la cartilla de la caja de ahorros donde al abrirla encontramos los ochocientos sesenta y seis euros de nómina mes tras mes

vuelven a presentarse con la misma situación cómo les décimos a esos ertzainas que su trabajo sigue mereciendo la pena

a todas las personas especialmente las personas mayores que después de cuarenta años de haber estado trabajando muchas veces de forma dura no tienen una pensión de ochocientos sesenta y seis euros una cantidad que a veces deben compartir

porque todos dependen de esa pensión qué les podemos decir a todos ellos les décimos que el sistema sigue siendo justo les décimos que la culpa es de quienes no quieren subir las pensiones que también qué décimos dar sin duda alguna respuesta qué les décimos a todas las familias a las que el gobierno vasco niega las ayudas a la conciliación familiar porque dicen para ti no hay porque no hay recursos pero sí hay para otras personas qué les décimos a todos ellos también a esas personas hay que darles una respuesta

a una señora mayor o a un señor mayor o a mí mismo si fuera el caso que se acerca a las oficinas de lanbide a solicitar

renta de garantía de ingreso porque la necesita y en

entre otras se reconoce que esa persona tiene un patrimonio tal valioso como una finca rústica que cultiva para tener unos tomates y si le dice

es causa suficiente para la exclusión son como digo situaciones cotidianas y al siguiente en la lista

sin más requisitos o simplemente porque no se tiene la constancia

en algún otro lugar qué se le puede decir a todo el mundo que comprueba

que nuestra tierra hay personas en situación irregular que desgraciadamente por esa situación tienen lo más parecido a un sueldo vitalicio de ochocientos sesenta y seis euros o similar porque

que para poder controlar maroto jauna mesedez isildu puedo continuar no

sí gracias señora presidenta como decía todo el mundo conoce que desgraciadamente

de las personas en situación irregular que solo pueden acceder a una situación diferente si consiguen tres años de empadronamiento solicitar el arraigo

y firmar y esto es lo más difícil un contrato de duración superior a un año teniendo en cuenta señor consejero el bajísimo éxito de intermediación que tiene lanbide

escasamente el dos por ciento si de cada cien personas en lanbide solo lanbide consigue intermediar en el dos por ciento de los casos aunque todos ellos sean personas en situación irregular

que la inmensa mayoría de personas en situación irregular obtienen desgraciadamente porque no pueden firmar nunca un contrato de trabajo algo así

entre todos qué le podemos decir a todas las personas que descubren que la mayoría del arco parlamentario en este parlamento

apoya precisamente contra el que lo denuncia declaraciones

directamente y en boca de sus portavoces reconocen que lo que realizan en nuestra tierra son empadronamientos ficticios en el caso de vitoria

con el objetivo de acumular la antigüedad suficiente para poder

cómo quieren que traduzcan los ciudadanos esta realidad sino como que alguien permite que exista una manera de ponerse el primero en la fila el primero en la fila de las ayudas sociales o el primero

en la sanidad pública sin ni siquiera vivir aquí y que cuando eso se denuncia como ha hecho el grupo popular la mayoría del arco parlamentario se ponen del lado

hasta el punto de que como ha sucedido con el partido socialista se presenta documentación adicional para complementar denuncia qué le podemos decir a los trabajadores de cualquier rango de entidades financieras que todos los meses comprueban

aparecen remesas a los países de origen un mes sí y otro también qué les podemos decir sabemos que por supuesto esto

y qué le podemos decir a todas las personas que observan con sorpresa no ha trabajado nunca pudiendo hacerlo gana más que quien ha trabajado siempre y eso sucede en demasiadas ocasiones porque el sistema

en un ejemplo concreto que yo desde luego no pude contestar

aquellas familias que viven en el mismo bloque un vecino arriba y otro vecino abajo el de abajo se levanta a las cinco de la mañana para ir a currar el de arriba todavía no se ha acostado

no tiene que firmar en las oficinas de lanbide yo decir el sistema de renta de garantía de ingresos es un sistema extraordinario y nosotros lo defendemos yo lo que quiero es que la inmensa mayoría de ciudadanos vascos

la mejor manera la mejor fórmula para hacerlo es precisamente mejorar el sistema para evitar que todo esto que sucede deje de suceder

entre todos los ejemplos que puedo poner también quería abundar en uno qué les podemos decir a todas las personas que observan con estupor que quién

es acusado de racista y xenófobo cuando he dicho públicamente y lo voy a repetir aquí que el color de la piel o el acento con el que se habla castellano o euskera no debe ser causa ninguna para la diferencia

inmigración no es igual a fraude qué se le puede decir a esas personas que también se sienten dolidas cuando alguien

cuando dicen como digo yo ayuda sí abuso no sea quien sea el que comete el abuso los que tienen ocho apellidos vascos qué pueden pensar y como sienten esas personas que comparten la manera de ver las cosas

cuando oyen esos calificativos a las mismas personas que como he dicho en otras ocasiones

tienen todo mi apoyo aquellos extranjeros que tienen el objeto de trabajar e integrarse exactamente igual que sucedió con miles de gallegos extremeños o andaluces que vinieron a esta tierra exactamente igual que hubo miles de nuestros abuelos que tuvieron que hacer lo mismo para conseguir una manera de vida pero que fueron o vinieron a eso a trabajar duro a trabajar duro para poder sustentar a sus familias en ningún caso ni aquellos gallegos extremeño o andaluces en el país vasco ni aquellos abuelos de nuestra tierra o de otras

se presentaban en la oficina de una institución a pedir como fórmula de vida una ayuda social

se me ha llamado racista y xenófobo y lo ha hecho el partido socialista en cadenas nacionales curiosas como pedir que se cumpla el reglamento de higiene y no se permita el acceso con ropa de calle a nadie a nadie

que se meten con ropa de calle eso genera también estupor pero lo que más estupor genera señorías es descubrir después de cuatro meses

simple y llanamente dan la razón a quienes tenemos esa manera de pensar que es defender a ultranza el sistema de solidaridad defender bien claro la renta de garantía de ingresos y precisamente por eso decir hay que mejorar el sistema y la norma para evitar que haya dudas

o abusos señor consejero yo creo que la manera en la que ha actuado en los últimos meses pone de manifiesto

por no querer ofrecer los datos que finalmente se han ofrecido sino que están en la hemeroteca declaraciones suyas consecutivas

primer día el fraude en la rgi es irrelevante segundo día

será del uno por ciento después después de verano hemos escuchado una de cada cuatro

al día siguiente se cifran esas cantidades en cincuenta y cuatro millónes de euros y a los pocos días lo mismo se cifra en setenta y dos millónes de euros

que tengan la dificultad de entender que hace falta garantizar un sistema de renta de garantía de ingresos para que efectivamente llegue a las personas

abusos quiero concluir diciendo que para legitimar el sistema

que persigue nuestro grupo hay que defenderlo pero no diciendo todo está bien

eso no aporta no aporta precisamente haciéndolo como hace usted desde el corazón hay que no solamente poner los medios que también persigue esta moción pero

para favorecer que haya dos inspectores más se trata y es lo que estamos pidiendo un cambio profundo

para garantizar que esas ayudas sean más justas para lograr que se llegue a las personas que de verdad

y señorías para garantizar que todos los vascos

que queremos dedicar esos recursos públicos a un sistema que funciona y que funciona cada vez mejor
los escandinavos maroto jauna amaitzen joan los escandinavos los escandinavos que no creo que tengan

ni de racista ni de xenófobo en ningún momento han diseñado un sistema que se parece

mucho a lo que tenemos en euskadi pero que tienen dos requisitos ampliamente aceptados por toda la sociedad danesa noruega o sueca para acceder a las prestaciones sociales

residencia legal y residencia habitual señor consejero tome esa referencia como un resumen de lo que está pidiendo nuestro grupo señorías

en muchos ámbitos nosotros que queremos extender esa solidaridad lo queremos hacer

gracias presidenta nosotros queremos inicialmente censurar

la campaña mediática impulsada por miembros del partido popular en euskadi para poner en cuestión el sistema vasco de protección social y especialmente la actitud

e inaceptable del alcalde de vitoria y parlamentario señor maroto que lejos de plantear un debate razonado sosegado y argumentado sobre medidas concretas para perfeccionar el sistema y reducir los niveles de fraudes existentes a preferido y son ya unos cuantos meses en declaraciones irresponsables demagógicas y populistas que han podido llevar y pueden llevar si no se detienen ya

de determinados colectivos a los que inicialmente señaló como responsables del fraude existente nosotros

del debate y sin insultar a nadie preferimos expresarlo en estos términos para que quede meridianamente clara nuestra posición al respecto y nuestra oposición a este tipo de campañas que lejos de solucionar los problemas

los agravan señor maroto y señores del partido popular si ustedes quieren defender la modificación del sistema vasco de protección social o la modificación en los términos que ustedes consideren de la ley de garantía de ingresos lo que deben hacer es plantear la propuesta en sede parlamentaria cosa que todavía no han hecho defenderla explicarla argumentarla y tratar de convencer a una mayoría de grupos parlamentarios esto es lo que un representante político serio debería hacer no hace en absoluto podrán obtener apoyos o no obtenerlos pero esa es la forma de se hable en que debe hacerse y el modo en que deben discurrir

señor maroto y señores del partido popular si ustedes consideran que existe fraude en las ayudas sociales deben aportar datos ciertos y contrastados y presentar las propuestas que ustedes consideren para reducir el nivel de fraude

es la forma en que pueden debatirse las cuestiones y además estoy seguro que si efectivamente se presentaran propuestas eficaces para acabar con el fraude

pero ustedes no han elegido el camino del debate político sosegado y argumentado sino la exageración

y la estigmatización de determinados colectivos generalizando en ellos el fraude de manera irresponsable y muy poco seria señor maroto y señores del partido popular de todo puede discutirse en la cámara

una pelea de barrio entreverada de mentiras y falsedades de exageraciones e inexactitudes y en el colmo de los despropósitos de afirmaciones xenófobas racistas e incendiarias señor maroto

no todo vale para lograr un puñado de votos claro que hay cosas que mejorar en el sistema vasco de protección social y en el funcionamiento de lanbide que ha sido lamentable

de empleo y claro que debe cumplir mejor mucho mejor su objetivo de la empleabilidad claro que todo es pero una cosa es perfeccionar el sistema vasco de protección social para fortalecerlo y ampliarlo que es lo que upyd plantea por ejemplo y otra cosa muy distinta cuestionarlo

y desde luego lo peor de todo es insistir en el camino de la demagogia y la exageración

la convivencia ciudadana usted señor maroto

absolutamente irresponsables durante los últimos meses señaló directamente a los magrebíes a los que acusó de no querer acusó a argelinos y marroquíes de no querer trabajar y de vivir de las ayudas sociales y afirmó que algunas nacionalidades viven de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar como si todos los ciudadanos de un determinado lugar actuaran de la misma forma además ustedes hablaron de inmigración masiva y de colonias enteras de inmigrantes que cobran las ayudas y del supuesto efecto llamada de nuestro sistema de protección social algo que es absolutamente falso de promover prejuicios y realizar este tipo de declaraciones todo representante político lo que debería hacer es impulsar la integración y la cohesión social

y otra cosa es incendiar la convivencia señor maroto una cosa es proponer perfeccionar el sistema y otra muy distinta estigmatizar a determinados colectivos de inmigrantes de manera claramente injusta e irresponsable una cosa es proponer mejoras para que el sistema funcione mejor y otra utilizar el racismo

una cosa es defender las ideas en las que uno cree y otra alentar el miedo al diferente que es lo que usted ha venido haciendo de manera insistente durante todos estos meses una cosa es denunciar comportamientos delictivos o el fraude y otra muy distinta

y el trazo grueso porque esto además deslegitima el sistema de protección social impide desde luego un debate serio riguroso argumentado y sosegado una cosa es utilizar datos concretos y otra muy distinta inventárselos manipularlos o utilizarlos en propia conveniencia

y por el bien de todos usted señor maroto señaló en un determinado momento que simplemente dijo lo que dice la calle

en lo que supuestamente dicen otros sino que lo que debe hacer es defender y explicar lo que usted efectivamente diga y plantee señor maroto y señores del pp más bien parece que ustedes no pretenden acabar con el fraude en las ayudas sociales sino directamente acabar con las ayudas sociales más allá de lo que usted haya venido a decir hoy aquí

un puñado de votos a cualquier precio en fin cualquier partido político está en su derecho de proponer medidas concretas para mejorar el sistema de protección social o medidas concretas para luchar contra el fraude existente sin embargo no es esto lo que pretende hacer ni lo que ha hecho el partido popular primero acusa

ni propone medidas para reducirlo luego dice que hay que cambiar el sistema pero seguimos sin conocer propuesta parlamentaria concreta para que podamos debatirla

que va a recoger firmas y presentar una ilp en lugar de presentar su propuesta en esta sede usted es parlamentario vasco puede presentar la propuesta que considere cuando quiera

y todo esto ya digo se ha hecho de manera irresponsable populista y demagógica señor maroto reconózcalo por favor todo esto se ha hecho para enfrentar a la ciudadanía y para tratar de pescar supuestamente unos cuantos votos de manera poco seria y nada rigurosa y de manera absolutamente irresponsable ya digo cualquiera podemos proponer una medida concreta para perfeccionar el sistema de protección social

no lo ha hecho es más ustedes han contaminado el debate durante largos meses y lo han hecho irresponsable pero voluntariamente cuál es de verdad su objetivo señor maroto y miembros del partido popular cuál es el problema que se destina mucho dinero a sufragar las ayudas sociales o que haya supuestamente mucho fraude ustedes que quieren acabar con el fraude sobre el que ni siquiera aportan datos o aportan datos erróneos

para desprestigiarlo también qué quieren cambiar el sistema porque haya fraude o quieren acabar directamente con el sistema para que no haya ayudas quieren perfeccionar el sistema de protección social o quieren recortarlo en nuestra opinión lo que quieren únicamente es utilizar este asunto para lograr un puñado

vergonzoso miren señores del partido popular y señor maroto ustedes utilizaron el término de jetas para insultar a una parte de la ciudadanía vasca obsérvense ustedes a sí mismos y a los miembros del partido popular que han delinquido durante los últimos años y ancho de españa si quieren hablar de fraude hablen de los defraudadores fiscales de sus defraudadores fiscales hablen de bárcenas hablen de los sobresueldos hablen de los sobres hablen de los de la gürtel

hablen de los de las tarjetas opacas hablen de todos esos

hablen de sus corruptos alcen la voz para cambiar lo que ustedes han hecho durante largos hablen de los delincuentes que anidan en su propio partido político hablen de sus propios delincuentes que por cierto son autóctonos

hablen primero de eso señor maroto qué décimos a tantos ciudadanos

es solo para quien ha intervenido muchas gracias señora presidenta el parlamento es

el foro de debate se preguntaba

qué sucede en la calle y por qué hay medidas como las que hemos propuesto ustedes hoy se destapan y se descubren

tres cosas y las tres no son ciertas han dicho

qué hacen ellos se ha explicado llevamos años tomando medidas

popular en los ayuntamientos que hemos gobernado para evitar empadronamientos irregulares para tomar medidas en busca

se ha dicho que es ahora cuando se toma la medida porque es una medida cómo era populista o electoralista llevamos años

mías desde hace un montón y la que quedaba por descubrir era la de hoy es por qué no traen esto al parlamento pues mire porque

es que lo que se pretende por parte de los grupos políticos en esta cámara es ventilarse el asunto cuando antes vamos a ver qué hacemos

no tomamos turno o a lo mejor nos organizamos una rueda de prensa conjunta luego vamos a hacer algo para pasar página cuanto antes

les molesta el problema es que les molesta mucho más a los ciudadanos en la calle que hoy van a quedarse atónitos de que la primera vez que se trae un debate con profundidad usando como portavoz a la persona que ha introducido este tema y a la que se le han dicho burradas como las que hemos escuchado hoy en esta cámara lo que hacen los grupos es pegar la espantada pegar la espantada

lo hicieron en el ayuntamiento de vitoria me lo hicieron como alcalde de la ciudad todos los grupos de la oposición se levantaron para dar la espalda al alcalde sin darse cuenta de que lo que hacían era dar la espalda a miles de vitorianos hoy lo que hacen es

y hoy en el parlamento lo que hacen es pegar la espantada y dar la espalda a miles de vascos que están pidiendo a gritos ayuda sí abuso no sea quien sea el que abuse no sé qué parte de todo esto se entiende creo que es completamente necesario que sepan una cosa en el día de hoy traer una propuesta para que ni siquiera la debatan para que ni siquiera entremos en el debate y para que se organice una rueda de prensa después sin derecho a réplica

políticamente cobarde sino que además también no es la respuesta que los ciudadanos están pidiendo no sé en cuántos debates se ha decidido no tomar la palabra pero hoy los vascos van a saber que efectivamente los grupos de esta cámara excepto el mío han tenido

porque sí está en la calle el debate de queremos ser solidarios pero no queremos abusos en nuestra solidaridad la respuesta es no hay respuesta señores

es armar el último argumento que necesitaba

para recoger las firmas que necesitan para que se evite

la fuerza de la calle y para que se deje de hurtar la voz de que queremos ser solidarios simplemente diciendo ayudas sí

volver a pedirle al señor maroto que por el bien de todos reflexione y cambie de actitud nada más eskerrik asko